tiene la palabra el señor secretario primero para proceder a la lectura del acuerdo del pleno del parlamento

al excelentísimo señor iñigo urkullu renteria y el real decreto

en sesión celebrada el día tres de septiembre de dos mil veinte y de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cincuenta y dos punto uno de la constitución

cuatro y cinco de la ley siete barra mil novecientos ochenta y uno de treinta de junio y ciento sesenta y cinco del reglamento del parlamento vasco ha designado presidente del gobierno vasco a don iñigo urkullu renteria

real decreto ochocientos ocho barra dos mil veinte de tres de septiembre

de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cincuenta y dos punto uno de la constitución y treinta y tres punto uno del estatuto de autonomía del país vasco

elegido por el parlamento vasco en la sesión celebrada el día tres de septiembre de dos mil veinte

orain askatasun guztien ikur den gernikako arbolaren azpian zina hartuko da acto seguido se procederá a la toma de juramento que se efectuará bajo el árbol de gernika símbolo universal de libertades

tiene la palabra el señor secretario primero lehendakariak

eta berak hala erabakita zina egingo du el lehendakari de acuerdo con sus convicciones y propia decisión va a prestar el juramento

artikuluak irakurriko ditu el secretario va a proceder a la lectura de los artículos veinticuatro y treinta y tres del estatuto de autonomía

se ejercerán a través del parlamento del gobierno y de su presidente o lehendakari artículo treinta y tres

y nombrado por el rey dos el presidente designa y separa a los consejeros del gobierno dirige su acción

y la ordinaria del estado en este territorio eusko jaurlaritzaren lehendakari jaunak du hitza bere kargua hartzeko
tiene la palabra el lehendakari del gobierno vasco para proceder a la toma de posesión

legeei errespetua gordez beteko dut nire lana por voluntad del parlamento vasco prestado el juramento

así como de la condición de representante ordinario del estado en su territorio que cumpliré con lealtad a la corona y respeto a la constitución el estatuto de autonomía de gernika